señoras y señores consejeros miembros del gobierno señor lehendakari señor lehendakari usted es lehendakari desde el pasado mes de diciembre y creo que es importante empezar diciendo esta frase porque a veces me da la sensación de que usted todavía no se ha dado cuenta de que usted es el lehendakari

responsable de las políticas que se han venido aplicando o de la falta de políticas que se han venido aplicando durante estos nueve meses de gobierno y de la toma de decisiones que se impulsen a partir del día de hoy da la sensación de que usted todavía no sabe que usted es el lehendakari porque en demasiadas ocasiones se pone de perfil

mira para otro lado por eso creo que es interesante empezar recordándole que es usted el lehendakari el máximo responsable de euskadi responsable de las políticas que se han aplicado en euskadi y que se vayan a impulsar en euskadi no olvide esto porque ya digo que a veces da la sensación de que

cuenta de este hecho estos nueve meses de gobierno se han

y su inacción política podemos definirlos como nueve meses perdidos para la ciudadanía vasca usted y ustedes

sin liderazgo y sin apoyos y se han venido negando durante largos meses a negociar y pactar

parlamentarios durante sus primeros meses de gobierno no logró fraguar los apoyos necesarios para lograr una estabilidad parlamentaria indispensable para poner en marcha las medidas que euskadi necesita y para trasladar la confianza y la certidumbre

justo en el peor momento de la crisis económica esto mismo se lo hemos venido recordando durante todos estos meses de legislatura usted

interpelaciones y otras iniciativas parlamentarias le hemos venido recordando absoluta soledad sus insuficientes veintisiete escaños para poder gobernar euskadi y su manifiesta incapacidad para buscar esos apoyos y fraguar esos acuerdos para poder impulsar aquellas políticas que euskadi necesita en un momento crítico de crisis política

se lo hemos venido recordando y usted efectivamente lo sabe bien le hemos venido exigiendo durante todos estos meses de legislatura que dialogara

que acordara que buscara apoyos que se diera cuenta de la situación en la que se encontraba y que nos explicara qué pensaba hacer qué políticas pensaba

para poder hacerlo obviamente después nos tocaría a nosotros la oposición parlamentaria

de esos acuerdos cuando se produjeran y la plasmación real y el seguimiento de los mismos en el día a día de la gestión política así han pasado nueve meses

solo en la más absoluta soledad sin apoyos paralizado inactivo y sin presupuestos un gobierno ausente y sin iniciativa

y a nosotros lógicamente nos toca analizarla y juzgarla efectivamente hoy podemos decir que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

ni de legislatura aunque de facto sea lo primero y parezca lo segundo en todo caso parece obvio que es un pacto que facilitará a su gobierno estabilidad parlamentaria y la aprobación de los presupuestos del dos mil catorce han llegado al escenario que ambos partidos

y han terminado firmando ese pacto que ambos partidos

dialogar negociar y pactar es indispensable en política nosotros mismos le pedimos que lo hiciera que dialogara que negociara que pactara que buscara apoyos usted y su gobierno ya tienen ese pacto con el partido socialista a nosotros más allá de quienes firman los acuerdos siempre nos han interesado los contenidos y el alcance de los mismos

los compromisos y la credibilidad de esos compromisos adquiridos y ya digo a nosotros nos toca posicionarnos políticamente ante el contenido de ese acuerdo que ustedes han firmado usted hoy por la mañana definía este acuerdo como un compromiso de gran entidad

en nuestra opinión estamos ante un matrimonio de conveniencia creo que lo resumió perfectamente el portavoz del grupo nacionalistas vascos

en este pacto hay una estrategia política efectivamente en nuestra opinión es un pacto para defender sus propios intereses partidarios

no es un pacto para modernizar euskadi ni para resolver los problemas de los ciudadanos es un pacto para dejar las cosas básicamente como están o al menos para dejar como están muchas de las cosas que deberían cambiarse

es un pacto que pretende sobre todo estabilidad y calma chicha parlamentaria ustedes justifican este pacto en la situación de crisis económica en la que nos encontramos

y teniendo en cuenta que la crisis económica no comenzó en julio sino hace cinco años por qué no lo firmaron antes la respuesta es obvia han firmado

ese acuerdo porque necesitan salvaguardar sus intereses de partido por un lado lograr estabilidad parlamentaria por otro lado tener presencia mediática pero en todo caso vayamos al contenido del pacto que ustedes han firmado

edukia baizik eta edukia aztertu behar dugu ustedes pactan una reforma fiscal usted decía antes por la mañana que ahora tenemos la oportunidad de pactar una reforma fiscal no la reforma fiscal

hace mucho tiempo la reforma fiscal podía haberse pactado hace muchos años y ha tenido que esperar hasta ahora una reforma fiscal en nuestra opinión era indispensable en euskadi

desde dos mil nueve y llevamos desde el año dos mil nueve dándonos de bruces con una mayoría parlamentaria que permanentemente se ha venido oponiendo incluidos ustedes tienen ustedes claro lo que su actitud de boicot

desde dos mil nueve reclamamos una reforma fiscal ya en diciembre de dos mil nueve planteamos la necesidad de recuperar el impuesto sobre patrimonio en álava y en bizkaia

o defender un mayor compromiso en la lucha contra el fraude fiscal hemos venido pidiendo desde entonces una reforma fiscal que tuviera como objetivo que paguen más quienes más tienen

y que garantizara más ingresos públicos para sostener el estado del bienestar y medidas de impulso de la actividad económica hemos venido pidiendo permanentemente que se pusiera en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y una mayor colaboración entre las haciendas forales

usted y su grupo siempre dijeron que no hemos venido pidiendo permanentemente un incremento de las sanciones y un incremento de los inspectores para luchar más y mejor contra el fraude fiscal

que no tenían otro objetivo que la elusión fiscal hemos venido criticando permanentemente el trato privilegiado de los deportistas profesionales y siempre nos hemos encontrado

aunque no solo es cierto del partido nacionalista vasco por lo tanto hemos venido pidiendo desde dos mil nueve una reforma fiscal para lograr una fiscalidad más justa y progresiva

y que pagaran más quienes más tienen ustedes siempre dijeron que no ustedes bloquearon cualquier posicionamiento de este parlamento para siquiera plantear esos objetivos y decíamos somos partidarios de que puedan incrementarse determinados impuestos pero para garantizar el estado del bienestar la sanidad

y las prestaciones sociales no para sostener el elefantiásico modelo foral actual no para sostener un gasto institucional a todas luces excesivo y desde luego decíamos priorizando en todo caso la lucha

hoy obviamente mantenemos el mismo discurso ustedes parece que defienden ahora una reforma fiscal que recoge algunos de los planteamientos que nosotros hemos venido

que no estamos de acuerdo con que se proponga un incremento generalizado de los impuestos para pagar los chiringuitos del partido nacionalista vasco o para mantener un entramado

y disparatado y ustedes efectivamente siguen manteniendo esos chiringuitos y mantienen el entramado institucional elefantiásico como luego explicaré desde que tenemos representación parlamentaria hemos venido reclamando que las competencias fiscales residan en este parlamento

de que los ciudadanos vascos paguemos distintos impuestos en función del territorio histórico donde residan desde que tenemos representación parlamentaria

dejen de estar en manos de las juntas generales y pasen a ser competencia de este parlamento ustedes con su pacto deciden mantener las cosas como están es por esto que el pacto fiscal que ustedes han alcanzado se ha negociado

y es por esto que para firmarlo ustedes han tenido en cuenta las mayorías políticas existentes en las juntas generales de los territorios históricos en este asunto por lo tanto nada cambia ustedes deciden no tocar el sistema foral

debata sí pero realmente no decida la fiscalidad nada cambia por tanto antes o después habrá en euskadi desarmonización fiscal porque el sistema

como si fuera una novedad cuando no lo es en absoluto por tanto el pacto que ustedes han firmado ni siquiera plantea que el parlamento vasco debata y decida la política fiscal se mantiene el disparate de seguir teniendo tres políticas fiscales para un territorio de apenas dos millónes de habitantes señor lehendakari obviamente es responsable el máximo responsable de que esto siga así y de que nada cambie desde que tenemos representación parlamentaria

ustedes se han posicionado permanentemente en contra a favor de las diputaciones forales a favor de la foralidad en contra de los ciudadanos y en contra de la lucha

en las diputaciones forales crear una comisión que elabore más adelante un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal un paso en la buena dirección pero claramente insuficiente

de este mismo año el grupo nacionalistas vascos planteó la creación de una comisión de lucha contra el fraude y no solo nosotros también el partido socialista de euskadi se opuso porque no era la mejor medida no era la medida más apropiada y usted

es responsable de que no se haya luchado más y mejor contra el fraude fiscal y es de que no se le den los pasos necesarios para luchar más y mejor

es el máximo responsable en su acuerdo dicen que el gobierno vasco en relación con el entramado institucional y la ley de territorios históricos elaborará un informe que será remitido a la ponencia parlamentaria correspondiente

que se ha reunido una sola vez en todo el año dos mil trece la ponencia de duplicidades básicamente acuerdan nada ningún compromiso salvo la realización de nuevos estudios y nuevas promesas y nuevas reflexiones para posponer y evitar las decisiones necesarias usted no propone

y usted es el máximo responsable como lehendakari usted no propone y decide mantenerlo

seguimos por lo tanto sin dar un paso para reducir las duplicidades y las ineficiencias de nuestro entramado usted no plantea ninguna sola medida

mira para otro lado decide que las cosas sigan como están el partido socialista de euskadi que durante la pasada legislatura votó en contra de incluir en el calendario legislativo la reforma de la ley de territorios históricos y el partido nacionalista vasco

negado a reformarla profundamente nos prometen ahora estudios ponencias y análisis sobre un asunto que es más viejo que la tana y usted se lava las manos nosotros no queremos más ponencias ni más estudios ni más análisis se trata de impulsar

cuanto antes y ustedes se niegan por lo tanto ninguna medida ni decisión concreta para reformar la ley de territorios históricos el partido nacionalista vasco

ni fechas exactas el entramado institucional y el gasto superfluo adherido a él y la desigualdad que sustentan por lo tanto

se lavan las manos como si no fuera un problema para euskadi y nosotros pensamos que sí lo es en relación al sector público societario nada decepcionante muy decepcionante no hay medidas concretas ni plazos para llevarlas a cabo solo promesas y evanescentes se mantiene todo básicamente como está no hay tampoco en la acción del gobierno ninguna medida de alcance solo parches y propaganda

sigue sin haber un compromiso claro y creíble de su gobierno para reducir drásticamente el número y la dimensión de los organismos públicos que conforman el voluminoso y opaco sector público societario seguirán siendo utilizados muchos de ellos para favorecer intereses particulares y partidarios y por ahí se nos irán

de euros necesitamos más transparencia en la política vasca y en nuestras instituciones sin embargo el mantenimiento de esta opaca administración paralela va en la línea contraria supone ocultación de información y datos a los ciudadanos y menos transparencia el gobierno no impulsa aquí ningún cambio

ambos partidos y su propio gobierno al fin y al cabo el partido nacionalista vasco

y el partido socialista de euskadi los mantuvo llevamos exigiéndolo años se posponen las decisiones no terminan de concretarse

el que ustedes han firmado para dejar las cosas básicamente como están

como está no se impulsan los cambios que euskadi necesitan se posponen nuevamente las decisiones necesarias es un pacto para proteger y salvaguardar

y que queda lejísimos de lo que euskadi necesita trasladar las competencias fiscales al parlamento vasco para garantizar la mayor igualdad posible entre los ciudadanos impulsar una reforma fiscal que fuera acompañada de reducción de gastos superfluo

impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal desde el propio gobierno y controlado por el parlamento e impulsarlo ya mismo sin comisiones intermedias que no sirven más que para enredar las cosas proponer una reforma profunda y ambiciosa de la ley de territorios históricos en lugar de alargar

decisiones indispensables o presentar una propuesta clara concreta concisa con plazos para reducir profundamente la administración paralela creada por el partido nacionalista vasco durante años y mantenida por los socialistas durante la pasada legislatura y presentar una ley municipal cuanto antes

responsabilidad suya y usted no puede ponerse de perfil lavarse las manos o mirar

usted es el lehendakari y es el máximo responsable de que estas medidas que nosotros consideramos absolutamente indispensables se pongan en marcha pero no parece que se vayan a poner ni mucho menos en los próximos meses en marcha o en los próximos años necesitamos

internamente y esto pasa por una reforma profunda del entramado institucional para alcanzar una distribución de competencias más sensata y acabar con las duplicidades y los inmensos gastos que siguen existiendo sistema que se ha mantenido durante años sistema mantenido por todos los gobiernos que ha habido también

es un sinsentido que una comunidad autónoma como euskadi de apenas dos millónes de habitantes tenga cuatro parlamentos tres políticas fiscales diferentes doscientos cincuenta y uno municipios

innecesarios usted es responsable de esto y usted será responsable si no impulsa las medidas necesarias cuanto antes para modificar toda esta

a lo realmente importante en lugar de destinarlos a mantener organismos inútiles o una estructura institucional absurda deberíamos dedicarlos a mantener

defender la sanidad la educación y el gasto social impulsar la economía productiva y ayudar a los emprendedores para de ese modo poder crear empleo estable y de calidad apostar por la competitividad el emprendizaje

hay que destinar los recursos públicos no a mantener instituciones inútiles o entes que no sirven absolutamente para nada tenemos

desempleados y un paro juvenil extraordinario se incrementa la pobreza se incrementa la desigualdad

falta de expectativas desahucios dramas personales y familiares situación evidentemente provocada por la crisis internacional

del gobierno de españa incluida la reforma laboral y una serie de recortes inaceptables e injustos pero también por las medidas tomadas por este gobierno vasco y

que ha sido o que está siendo un año muy duro para los consejeros yo creo que está siendo un año muy duro especialmente para los ciudadanos que están atrapados en una situación de crisis económica durísima estos son en nuestra opinión los grandes problemas que resolver usted plantea una serie de medidas por otro lado para la reactivación económica y la creación de empleo algunas podemos compartirlas

ni planes para crear empleo temporal o precario ni obras innecesarias o faraónicas o parches nada de eso apoyaremos pero si vemos que ustedes aplican una serie de medidas necesarias para salir de la crisis para crear empleo para reactivar la actividad económica nosotros le apoyaremos pero ya digo no

o no estable en fin nuestra conclusión respecto al pacto que ustedes han firmado es que es básicamente lo que pretenden más allá de determinadas medidas positivas que pudieran percibirse es salvaguardar sus intereses partidarios evitar que nada importante cambie y asegurarse como le decía al principio calmar chicha parlamentaria estabilidad parlamentaria

y la estabilidad parlamentaria son positivos de hecho pienso que son absolutamente indispensables pero cuando su objetivo es proteger los intereses de los ciudadanos e impulsar las políticas necesarias no cuando pretenden que nada importante cambie o dejar todo básicamente como está

no necesitamos maquillajes ni reformas cosméticas para evitar que cambie lo que debe radicalmente cambiarse sino insisto una modernización profunda y radical del sistema institucional del país vasco y de sus estructuras más arcaicas y obsoletas cosa que este pacto evita y usted

de impulsar en euskadi ha habido todo tipo de pactos durante los últimos treinta años ninguno de ellos ha impulsado estos cambios pues bien en nuestra opinión estos son los cambios más urgentes que euskadi necesita en todo caso y esto es importante cualquier medida que vaya en esa dirección y que no sea

es dar por bueno un pacto cosmético firmado por dos partidos políticos que cuando han podido no han movido un dedo sino todo lo contrario para impulsar estas

impulsar estas reformas para modernizar internamente euskadi

crear empleo estable y de calidad dedicar los dineros públicos a lo verdaderamente importante y atender las necesidades de los ciudadanos para nosotros

de los próximos meses y de los próximos años y usted no ha dado muestras sino todo lo contrario de querer impulsarlos quiere dejar básicamente todo como está

insistimos en que usted es el máximo responsable y debería porque puede hacerlo todas estas reformas usted hoy por la mañana nos ha planteado un nuevo estatus político nueva propuesta de futuro político para euskadi

yo tengo que decirle que tendrá que concretar qué es lo que usted quiere

no mirar tanto a los demás o lo que vayan a proponer los demás sino qué es efectivamente lo que usted desea cuál es el nuevo estatus político que usted defiende o defendería para euskadi y usted no lo ha hecho se ha puesto de perfil

qué nuevo estatus político defiende usted para euskadi porque este es un asunto absolutamente fundamental para los ciudadanos vascos para garantizar la convivencia

cuanto antes no lo concreta lo esconde no se ha atrevido a decir qué nuevo estatus defiende usted ha mirado al resto de grupos parlamentarios pero usted se ha vuelto a olvidar que usted es el lehendakari por lo tanto le pedimos que concrete qué nuevo estatus político defiende usted para euskadi cuándo quiere ponerlo en marcha y cuáles serían las características de ese nuevo estatus y qué

no lo ha hecho no ha concretado vaya por delante tendrá usted y su gobierno en frente a upyd si lo que pretende es saltarse

no respetar la constitución española o impulsar iniciativas políticas para romper la convivencia entre vascos o de los vascos con el resto de los españoles

el derecho a decidir es una falacia la consulta es inaceptable no se puede fraccionar el censo electoral la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos españoles no admitiremos

si quieren proponer la reforma de la constitución española vayan al congreso y defiéndela allí pero en todo caso insisto díganos usted

cuál es el nuevo estatus político que defiende para euskadi tiene usted que concretarlo en todo caso nosotros no vamos a rehuir el debate en torno a lo que usted define como encaje de euskadi en el resto de españa nosotros no vamos a ponernos de perfil vamos a presentar

nuestros argumentos por decirlo claro no vamos a formar parte de ninguna mayoría o minoría silenciosa vamos a hablar claro

defender los mismos argumentos que hemos defendido ante este nuevo estatus político con el que usted nos amenaza pero que a la vez que nos amenaza se esconde y no se atreve a plantearla si queremos hablar si ustedes quieren hablar del encaje de euskadi en españa ya digo nosotros no vamos a callarnos vamos a defender como siempre lo hemos la reforma del estado autonómico

defender la configuración de un estado federal simétrico y cooperativo conformado por comunidades autónomas todas ellas

vamos a defender la igualdad de todos los ciudadanos españoles vamos a defender la igualdad fiscal vamos a defender la reforma de todas las leyes que sean necesarias para garantizar estos principios y para defender la mayor igualdad

españoles vamos a defender ya lo hemos hecho y lo haremos sin complejos porque ya le digo que no vamos a callarnos vamos a defender la supresión de las diputaciones provinciales y vamos a proponer la supresión de las diputaciones forales y vamos a proponer la fusión de municipios todo esto con el objetivo de garantizar

estado del bienestar posible y el bienestar de los ciudadanos todo esto para modernizarnos internamente para salir de la crisis para defender más igualdad y para defender más unión y menos separatismo

cuál es el nuevo estatus político que defiende para euskadi nosotros vamos a defender estos principios

los argumentos efectivamente en euskadi existe otro problema nos queda lograr la derrota definitiva e incondicional de eta nos queda lograr la derrota de eta sin que se produzca

de impunidad y para lograrlo nosotros hemos planteado veinte principios

upyd al plan de paz y convivencia de su gobierno y supongo que habrá ya leído y estudiado cuáles son esos veinte principios que plantea

nosotros defenderíamos un pacto democrático entre todas las fuerzas políticas democráticas para alrededor de estos principios lograr una serie de objetivos absolutamente irrenunciables lograr la derrota definitiva e incondicional de eta garantizar que no habrá

para los terroristas garantizar que trabajaremos unidos para deslegitimar a eta y su historia y garantizar que elevaremos el listón de la exigencia democrática

no puede ser considerado un partido político democrático y respecto

en fin no sé si merece la pena que insista sobre la posición política de upyd porque no ha cambiado y mantenemos nuestra coherencia lo dijimos desde el principio

no sirve para derrotar a eta resquebraja la unidad democrática como lo estamos viendo en las últimas semanas legitima a eh bildu y servicios auxiliares

de la banda y solo iba a servir para hablar y tratar de los asuntos que interesan a batasuna básicamente política penitenciaria e impunidad

nosotros les ofrecemos nuestros veinte principios para poder firmar un pacto democrático entre las fuerzas políticas democráticas aquí presentes

en el parlamento vasco estas son nuestras recetas por lo tanto para lograr la derrota definitiva de eta en fin señor lehendakari voy terminando

así vemos a su gobierno y así vemos el pacto que ustedes han firmado con el partido socialista de euskadi y en fin ahí están también los principios y los objetivos y las reformas que upyd plantea para atender de la mejor manera posible a los ciudadanos vascos especialmente aquellos que están en peor

es fundamental en estos días que corren reivindicar la política en mayúsculas pero la política que sirve para cambiar las cosas la política que sirve para cambiar las cosas la política transformadora la política valiente la política

y la política al servicio de los ciudadanos es la hora

la política pero insisto política para cambiar las cosas

hay muchísimas cosas que deben cambiarse nosotros trabajaremos para ello muchas cosas se pueden y deben hacerse hace falta voluntad política

pero no puedo hablar de esfuerzos lehendakari cuando miro atrás y veo qué es lo que su gobierno a hecho

vayamos a los datos en diez meses su gobierno ha presentado dos proyectos de ley dos uno sobre las pagas extraordinarias

ha aprobado quinientos setenta y nueve decretos ley cuatrocientos ochenta y cinco de los cuales son nombramientos

el ochenta y tres por ciento de esos decretos dedicado a nombramientos y ceses fin del balance de su iniciativa legislativa

sí pero convendrá conmigo que a pesar de ellas ustedes podrían haber arriesgado más podrían haber hecho más se esperaba más

gobernar hoy significa gestionar la escasez sencillamente porque no hay dinero y puesto que los recursos son limitados y escasos y las necesidades muchas y urgentes hay que tomar decisiones lo importante ya no es todo lo importante es

si queremos ser claros y honestos con los ciudadanos debemos decirles la verdad que nuestra obligación la suya es ser eficaz con poco

fue de cero cero euros y por tanto el problema al que nos enfrentamos los vascos y la política radica

cómo hacemos las cosas y ese cómo se hace desde la realidad y por eso no entiendo muy bien por qué sigue jugando lehendakari a anunciar planes que no se cumplen que confunden cuántos de los planes anunciados a lo largo de estos meses ha puesto en marcha lehendakari

se acabó la época de abundancia pero no porque sea yo una agorera

por muy dura que sea lehendakari ponga los pies en el suelo y gestione una realidad difícil de recursos limitados no prometa lo que no tiene mire de frente a los vascos y dígaselo

podemos y debemos aspirar desde las instituciones a ser modernos en la escasez de hecho está siendo ya una época dorada para aquellos que buscan la optimización de lo escaso y sin embargo

de euskadi como si esos cuatrocientos millónes de euros más que nos llevaremos al lastre al plomo de la deuda

para hacer algo pequeño que le permita lucirse ante la opinión pública no

lo mejor para los vascos no resolvemos gran cosa tenemos los vascos en estos momentos

cuando hace apenas unos años la deuda vasca era de cuatrocientos millónes

de remanente quién nos ha visto y quién nos ve nork esango zigun euskaldunoi

nola gauden orain no estamos precisamente para alegrías y lo decía usted esta mañana estamos en el peor momento estoy de acuerdo con usted mientras otros van poco a poco saliendo del agujero aquí seguimos perdiendo empleo

en paro es una desgracia es verdad que esa tasa

es mucho menor que en otras zonas de españa pero no es ningún consuelo no lo es porque además euskadi es la comunidad donde más ha crecido el paro en lo que va de año superando en más de dos puntos a extremadura que es la siguiente

que no lo digo por meter el dedo en el ojo a su gobierno lo que digo lo digo porque me duele y sé que le duele

esa debe ser nuestra prioridad recuperar a esos ciudadanos recuperar su trabajo que es lo mismo que recuperar su dignidad y su vida

y su gobierno es que el partido popular vasco siempre le apoyará en todas las medidas para salir de la crisis porque para nosotros

no tiene precio político una de las lecciones de la crisis es que siempre las pagan los ciudadanos

con el esfuerzo de los ciudadanos y la sociedad vasca tiene afortunadamente todos los resortes para poder afrontar esta etapa dura

pero es en ellos donde está nuestra fuerza es en la fuerza de nuestros trabajadores

en el esfuerzo colectivo de tantas y tantas personas que con muchísimo sacrificio

y con empuje sacan adelante el país es en ellos donde reside nuestra principal capacidad para salir de esta y nuestra obligación es facilitarles su labor y darles el protagonismo que se merecen porque el crecimiento del país vasco será el resultado del esfuerzo de esas personas

el de los políticos nosotros podemos ayudar y no deberíamos dificultar la realidad de lo que estamos viviendo en euskadi por esta breve radiografía que le expongo no es muy diferente desgraciadamente

nuestra capacidad de gestión todo el mundo lo sabe está muy condicionada por el contexto en que desarrollamos nuestra actividad y para gobernar me parece importante ser consciente de los límites de la realidad es consciente usted de esos límites se lo pregunto porque no sé si eso lo compartimos o no señor lehendakari se lo pregunto porque piensa de verdad que nuestro futuro el de los vascos

es eso lo que persigue con el nuevo estatus político para euskadi mire el tejido empresarial

funciona gracias a sus alianzas estratégicas nuestras empresas son proveedores de otras grandes

merkatuen boterea eta eragina ematen du el poder y la influencia lo dan la dimensión el tamaño y una sociedad como la vasca con dos millónes de habitantes por muy bien que vaya su economía no representa ni siquiera el diez por ciento del producto interior

por tanto qué persigue con el nuevo estatus político para euskadi dónde vamos los vascos sin esas sinergias necesarias sin el volumen

sin la dimensión que nos da españa cómo nos moveremos por el mundo

el problema al que nos enfrentamos los vascos no es el de los sentimientos sino

y difícilmente saldremos de la crisis si no aclaramos y coincidimos en que el destino que queremos para el futuro de euskadi es su participación activa en europa

es la segregación de los pueblos en europa harrotasun kontu horiek txikitasun kontuak ikuspegi itxikoak

erakusten duen moduan la vía catalana no puede ser la vía vasca los vascos hemos sufrido mucho en el pasado no nos merecemos sufrir la exaltación de sentimientos

del independentismo si a eso es a lo que se refiere con lo de un nuevo estatus para euskadi también en eso le pedimos liderazgo

los retos del futuro le pido lehendakari que no estreche el camino del progreso de los vascos reavivando debates del pasado

es que de esta crisis no vamos a salir solos sino cooperando colaborando coordinando de esta crisis saldremos juntos

pero eso no significa que seamos idénticos para nosotros para el partido popular

abierta de ciudadanos vascos el reto que tiene euskadi por delante es demasiado importante para reducirlo a los retos que tengan sus partidos el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

no están necesariamente vinculados con los intereses del país como lo demuestra un pacto que a nuestro juicio va detrás de la dinámica de euskadi entre otras cosas si se consolidan las expectativas para dos mil catorce y dos mil quince

un escenario en el que el país vasco debería estar trabajando un escenario de mejora en las expectativas de competitividad de nuestras empresas

cuyo objetivo no es recaudar sino favorecer y estimular el desarrollo económico y la prosperidad social en euskadi sin embargo en lugar de aplicar una reforma fiscal decidida lo que se baraja ahora es una subida impositiva

de estímulo es decir al revés y a la contra de lo que exige el momento por eso creemos que es un error este pacto fiscal

porque si no hay empleo no hay irpf si no hay consumo no hay iva sin beneficios no hay impuesto de sociedades

debemos crear empleo necesitaremos ponérselo más fácil a quienes lo crean o es mejor penalizarles para recaudar más y otra cosa ese continuo esfuerzo que se demanda a los ciudadanos a autónomos a empresarios

por qué se invaden competencias qué pasa con esas sociedades públicas que no generan valor convertidas en refugios clientelares la política fiscal que necesitamos en euskadi debe ir enfocada al crecimiento económico

errespetatu behar dena por eso me choca tanto este pacto fiscal quitar la desgravación de vivienda es quitar al que más tiene

al que le queda algo o por seguir con las preguntas qué le parecen estas

cómo se ha estimado la cifra de mil quinientos millónes de euros que podrían obtenerse con la reforma fiscal cuál es el fraude fiscal que se va a perseguir

profesionales liberales todos a la vez con qué medios con qué instrumentos y añado qué novedad es esta de perseguir

acaso no han tenido responsabilidades ninguno de los firmantes en las haciendas forales vascas

qué es eso de que el parlamento vasco acuerde la fiscalidad vasca el parlamento vasco ni ha sido diseñado para ni puede sustituir a las juntas generales no podemos sacar de la crisis a euskadi desarticulando euskadi

eso es lo que hay que respetar nos sorprende la posición de su gobierno lehendakari y la posición de su partido sobre esta cuestión

lo que no se consigue en bizkaia en gipuzkoa y en álava

distintas en el parlamento vasco porque sería tanto como despreciar la soberanía de vizcaínos guipuzcoanos

el parlamento vasco tiene otro marco competencial se lo dije antes lehendakari para el partido popular vasco salir de la crisis no tiene

nacionalista o no nacionalista hay otros matices que son importantes

yo defiendo que juntos tenemos que resolver los problemas y que cada uno tiene que aportar su parte de responsabilidad para que los ciudadanos de los que dependemos puedan hacer su propia vida en las mejores condiciones posibles

compromisos como el que le ofrecí para alcanzar un acuerdo de estabilidad económica política y social para euskadi

el gran acuerdo para la euskadi del siglo veintiuno también creo en la cultura del pacto creo en la necesidad de responder

y nos pregunta cuándo os vais a poner de acuerdo creo que ha llegado el momento de profundizar en lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa

un gran pacto que vaya más allá de las sumas políticas de mayorías o de las premuras de un gobierno lehendakari debemos ser capaces de ofrecer a esta sociedad lo que ha sido imposible durante tantos años estabilidad

y dialogo sin intereses de por medio codo con codo

que mejoraría el presentado por ustedes que garantizaría el modelo de bienestar

que hay que preservar y poner en valor creo lehendakari que con este gran pacto empezaríamos a dejar atrás una etapa muy difícil

el presente está siempre abierto por unas ausencias injustificables el terrorismo de eta decidió arrebatarles la vida

y así despojarnos a nosotros mismos para siempre de su relato faltan las víctimas esa es la verdadera tragedia vasca

es ponerles en su verdadero sitio en euskadi siempre faltará algo siempre faltará alguien las víctimas de un terrorismo sin sentido las víctimas del terrorismo de eta son la pieza que falta en euskadi es la solución

en otra parte y es cierto la vida sigue cada uno de nosotros procuramos que la vida continúe con todas sus dificultades refugiándonos en nuestra pequeña normalidad y nada nada de eso significa

la vida fluye pero el recuerdo permanece nada ni nadie podrá mentir y refugiarse en la amnesia interesada para ocultar qué ocurrió en euskadi

no hay mayorías políticas ni intereses políticos que puedan condicionar la realidad de lo vivido que no se le olvide a nadie

responsabilidades ni es justa ni es real

de nadie yo nunca colaboré con nadie ni yo ni mis compañeros hicimos nada para que mataran a nadie ni yo

ni nadie para asesinar vilmente como eta hizo a ciudadanos inocentes a trabajadores inocentes a políticos inocentes a periodistas inocentes a abogados inocentes a policías o militares o empresarios que lo único que hacían

con las obligaciones propias de sus cargos y me revienta que algunas formaciones políticas no entiendan que este horror el que hemos vivido no tiene equidistancias posibles

no tiene justificación alguna que nada ni nadie puede tomarse la justicia por su mano como hizo eta

necesitamos acuerdos comunes entre demócratas para asentar lo obvio

para olvidarnos del pasado desde el recuerdo y eso solo lo podremos hacer

hacia a quienes se niegan a asumir su responsabilidad si la exigencia democrática se vuelca sobre los que aún se resisten a reconocer el estado de derecho y la democracia

no se trata de que se imponga el relato del partido popular el relato del partido nacionalista vasco el relato de los socialistas el relato de la izquierda abertzale lo que se tiene que imponer

de lo ocurrido lo que se tiene que imponer en la política es lo que ya se ha impuesto en la sociedad en esa misma sociedad que sabe y recuerda lo que sucedió o en tantos lugares que sabe y recuerda

qué hicieron algunos y qué hicimos la mayoría y cuando hagamos eso quienes nos dedicamos a la política cuando asumamos la verdad sin tacticismos ni intereses políticos

reparando las heridas del pasado tratando de hacer vida normal aunque muchos ya no la podrán hacer

sé que no son unas necesidades cualquiera ni siquiera necesidades

necesidades para que los miembros del partido popular nos sintamos mejor

son una necesidad para el conjunto de la sociedad vasca una necesidad para la convivencia una necesidad para poder seguir prosperando

una necesidad para enfrentarnos y mirarnos ante el espejo de lo que fue el país vasco sacudido por la brutalidad el horror el sinsentido y mirándonos a ese espejo podamos reconocernos

muy pocos vascos que decidieron ponerse el mundo por montera y manchar el buen nombre de lo vasco los vascos no somos así eta

ni nos representará jamás y puesto que ningún vasco de bien se siente representado por eta rompamos los vascos definitivamente con todo su horror exijamos a los que se resisten aún a reconocerlo

que rompan amarras y digamos claramente que lo que pasó reconozcámoslo diciendo claramente todos todos los vascos

fueron eta y sus cómplices ese será el inicio del fin de esta pesadilla el inicio de una euskadi que vuelva a presumir de todo lo bueno que tiene una euskadi

que unos pocos emborronen su nombre estas son

nuestras aportaciones a su plan para la convivencia no podemos construir la convivencia por el tejado sin asentar cimientos sólidos y concluyo

el futuro depende de nosotros se acabó eso de buscar culpables fuera de reclamar y desairar aquellos con los que tenemos y debemos colaborar cooperar como lo hacemos con el ministerio de industria en el delicado asunto de los astilleros

tienen futuro vamos a pelear por él y no lo podremos hacer solos lo haremos en colaboración con el gobierno de españa que es lo mejor para todos

si queremos prosperar y ser líderes si queremos salir de la crisis

lehendakari le cojo el guante de la transición la nueva transición en euskadi pasa por recuperar nuestra capacidad para crecer para crear empleos para invertir innovar emprender y volcarnos en nuestros jóvenes

con el futuro y eso nos obliga a asumir los nuevos tiempos

asumamos con naturalidad incluso con agrado que la ciudadanía es cada vez más exigente mucho más exigente consciente de sus derechos y pide soluciones para todos los problemas

le pido ambición lehendakari es tiempo de tomar decisiones el liderazgo es muy importante

para tejer pactos de alcance liderazgo para adaptarse a los tiempos liderazgo para construir entre diferentes liderazgo en definitiva para salir de esta como sabemos los vascos con firmeza y responsabilidad muchas gracias

en una situación radicalmente diferente a la que existía antes de que se suscribiera el acuerdo para conseguir una euskadi más moderna solidaria

usted señor lehendakari se presentó en este parlamento solo y con propuestas que solo respaldaba

por haber buscado acuerdos con otros grupos para gobernar entró solo y salió solo

y ya entonces le dijimos que se equivocaba que euskadi necesitaba un gobierno fuerte y estable algo que por cierto usted mismo había reclamado con insistencia

de lo que exigía a los demás le dijimos también que en una situación de grave crisis económica como la que estábamos padeciendo era imprescindible sumar fuerzas era imprescindible tener objetivos claros compartidos propuestas nítidas y concretas que fueran a la raíz de los problemas para dar esperanzas seguridad y soluciones a la gente que lo estaba pasando mal

con el menor apoyo y la mayor debilidad de toda nuestra historia y esa fue una mala noticia

y para la sociedad vasca y ese mismo día ese mismo día lehendakari no el veintiuno de mayo que no fue el día fundacional de nada de esa reunión salimos como entramos sin saber lo que se pretendía

yo ya propuse espacios para el entendimiento le propuse acuerdos de país para hacer frente a nuestros problemas colectivos

le hablé ahora que parece que todo el mundo se apunta a ello allí ya le hablé de acordar una reforma fiscal y de planes para la creación de empleo y la defensa de la economía productiva de la sostenibilidad de los servicios públicos de la modernización del país y de su entramado institucional lo que pasa que entonces no obtuvimos ninguna respuesta más allá

que evidenciaba cómo querían gobernar es decir que iban a pasar de una oposición que había bloqueado e impedido cualquier tipo de acuerdo a un gobierno que

pretendía imponer sus políticas sin ningún tipo de discusión

nueve meses que solo se pueden calificar de nueve meses perdidos ni una sola ley

ni un solo plan fuera del recorta y pega sobre todo recorta de anteriores propuestas y planes y por último pretendió

y no nos pidió apoyos parlamentarios negociados sino adhesiones ciegas

y por primera vez en nuestra historia democrática fue el propio gobierno su gobierno el que tuvo o retiró esos presupuestos

han intentado gobernar en solitario sin contar con el resto de las fuerzas políticas pero solo ha conseguido

y no es lo mismo porque gobernar un país no es estar en el gobierno gobernar en un país es tener un proyecto es articular los acuerdos suficientes y es obtener los recursos necesarios para llevarlo a la práctica pero les ha costado mucho darse cuenta de su error

que la mera presencia del pnv en el gobierno iba a arreglar todos los problemas del país que la economía se iba a reactivar sola que el paro que durante toda la legislatura anterior criticaron como el resultado de la gestión socialista se iba a arreglar por sí mismo pero ha resultado que no usted mismo ha dicho esta mañana que vamos a acabar el año

bueno el problema es que en lo que llevamos de año se han destruido ya

menos en la seguridad social y ese es el dato francamente preocupante y los datos socioeconómicos siguen siendo malos

lejos de irse arreglando se han ido agravando hoy tenemos más de ciento setenta y tres mil parados y paradas el desempleo sigue creciendo

en un año se ha duplicado el número de expedientes de regulación de empleo y el número de trabajadores y trabajadoras afectados por ellos el turismo que conseguimos que alcanzase cifras históricas en la pasada legislatura ha descendido

para el resto de españa ustedes solo tenían una obsesión romper con la estrategia del anterior gobierno romper con la marca españa que les recuerdo que es la primera potencia mundial turística

el comercio minorista ha recogido la mayor caída de toda españa y algo tendrá que ver

el que su gobierno redujese en un noventa por ciento las subvenciones y las ayudas para la modernización y para la dinamización del sector

por ciento se han agotado las ayudas de emergencia social algo que puede ser normal en tiempos de crisis ahora lo que no lo es es que su gobierno decida no ampliar

para que muchas familias de euskadi puedan salir adelante y cubrir sus necesidades básicas más de trescientos mil trabajadores y trabajadoras de este país

y ustedes siguen sin entender la necesidad de poner una mesa de diálogo social que abandere el impulso de esa negociación colectiva tan necesaria la deuda

al anterior gobierno socialista es hoy bastante mayor que cuando tomó posesión de su cargo y además desde el primer día han intentado obtener mayores márgenes de endeudamiento y no es que me parezca mal cuando la deuda tienen objetivos claros lo que denunciamos es que lo que antes criticaban tan duramente ahora sea

solo hayan destinado ciento treinta a inversiones productivas se acuerdan de lo que decían cuando eran oposición

en estos meses han aplicado el copago farmacéutico perjudicando a los más vulnerables ahora dicen que tal y como exigió este parlamento se lo van a compensar

han llevado al limbo la fuente de espalación frenando una de nuestras apuestas científicas más importantes han incumplido el plan universitario han paralizado

que podían ayudar a nuestra reactivación económica estos son los datos de la tozuda realidad y solo nos dicen una cosa evidente

un mal año ha sido un año perdido en la lucha contra la crisis porque no ha habido iniciativas para combatirla vea si no este propio parlamento

en los grupos de la oposición y es que salvo la ley para adelantar la paga extra a los funcionarios ustedes van a cerrar este año en blanco y mientras tanto este parlamento trabaja ya en cuatro leyes propuestas por los socialistas vascos porque el partido socialista de euskadi

y sabe también estar en la oposición ofreciendo alternativas y ofertando y buscando entendimientos

lo que hemos hecho y por eso nueve meses y una semana después iniciamos este nuevo curso de una manera bien distinta

por las expectativas abiertas con el acuerdo de país que hemos alcanzado y que el pasado lunes firmamos

es un acuerdo que pretende impulsar la economía productiva y crear empleo

el sostenimiento de los servicios públicos esenciales reformar nuestro entramado institucional luchar contra el fraude impulsar una reforma fiscal

cuando se van a empezar a hacer las cosas que necesitamos y la demostración de lo que digo es su propia intervención de esta mañana

buenas intenciones planes que están a punto de concretarse pero que no se han puesto en marcha todavía ninguno de ellos intenciones que se llevarán a la práctica pero nada de lo hecho ninguna medida nueva que hayan puesto en marcha en este tiempo más allá como le decía antes de la copia de medidas anteriores pero con presupuesto

a este parlamento sin acabar de hacer lo suyos

de la firma del acuerdo que hemos suscrito el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco quiero decir que es un acuerdo de progreso al que se pueden sumar

esos objetivos ese acuerdo es la demostración de la utilidad de la política cuando se pone al servicio de la sociedad es la demostración

sí había alternativa es más de hecho el acuerdo es casi una enmienda a la totalidad a ese presupuesto en ingresos en servicios públicos

esta tiene que ser la de la recuperación económica y la generación de empleo la de la modernización de euskadi y de sus instituciones

una buena base para la recuperación económica y la generación de empleo en euskadi no es baladí que vayamos a destinar en los próximos años

de euros para la reactivación económica para las ayudas a las empresas

su primer empleo los pequeños comercios vascos que están viviendo una lenta agonía en muchos casos van a tener ayudas de las instituciones públicas

se van a poder crear nuevas empresas de emprendedores y modernizar las que ya tenemos vamos a disponer de una fiscalidad más justa progresiva y suficiente

y eficaz en euskadi y cuando poco a poco empecemos a percibir los síntomas de la recuperación podremos decir que este acuerdo marcó la senda para ello

definitiva y radicalmente en nuestro país porque por primera vez este parlamento va a definir la fiscalidad básica y común para toda euskadi

que establece objetivos para todas las instituciones competentes

para perseguir mejor al defraudador estamos proponiendo una reforma fiscal razonable y justa para poder sostener nuestro modelo económico

que pague todo el mundo lo que le corresponde sin que nadie se escape por los vericuetos de la ingeniería fiscal

que sea una fiscalidad suficiente que este armonizada en toda euskadi

lehendakari que tendrá que tener y ahora bien quién se puede oponer a esto

porque desde luego yo no lo entiendo no es verdad por mucho que alguno se empeñe en decir lo contrario que este acuerdo suponga una subida generalizada de impuestos le diré es verdad va a afectar a alguna gente afectará a los que ganan más de noventa y uno mil euros van a afectar a los que pueden

a sus planes de pensiones va a afectar a los que pagan menos por sus rentas de ahorros que lo que pagan los trabajadores con su nómina entonces de quién estamos hablando de quién estamos hablando

de ninguna manera buscamos que paguen más los trabajadores las trabajadoras o las clases medias porque le diré una cosa lo que sí es un atentado contra los bolsillos de los trabajadores y de las clases medias es el copago lo que sí es un atentado contra esos bolsillos es la reducción de becas

y es la reducción salarial es la política de recortes que carga sobre esas espaldas todas las consecuencias de la crisis nuestra reforma fiscal es justo para lo contrario porque usted dice que hay vida más allá de los clichés

ya pero mientras sea la derecha

con dignidad porque será esclavo de la necesidad a lo que ustedes lo están arrastrando

así es si quiere luego debatimos y hablamos de las personas que no pueden seguir pagando la carrera de sus hijos

de la privatización de la sanidad que está expulsando a colectivos enteros de la atención universal

me siento muy orgulloso de presentar una reforma fiscal

de una vez los que más tienen los que hasta el día de hoy

que se habían ido poniendo en este país y ya está bien es una reforma

lógica justa equitativa y razonable para que pague más quien más tiene y para intentar que nadie se escape sin pagar lo que le corresponde y eso lo defiendo

con orgullo pero este acuerdo va más allá porque en él se recoge el compromiso de que nuestra arquitectura institucional va a ser sometida a debate

para evitar duplicidades y despilfarros un reparto de las competencias más riguroso más claro más razonable vamos a abordar por fin después de treinta años de retraso el tener una ley municipal en euskadi antes de que acabe dos mil catorce

para hacer un país más moderno más cohesionado más racional antes de terminar dos mil quince por cierto la política para racionalizar y hacer eficiente el entramado público vasco no lo ha empezado esta legislatura lo empezó la anterior por supuesto

era imprescindible que los servicios públicos siguieran garantizando la igualdad de oportunidades especialmente en los servicios de sanidad

que recoge la garantía de que se va a destinar la misma financiación los mismos recursos

para el sostenimiento y funcionamiento de los servicios públicos en educación en sanidad y en políticas sociales

el mantenimiento de las grandes reformas que impulsamos los socialistas

la formación profesional la estrategia de crónicos el desarrollo las inversiones en atención primaria hospitalaria investigación innovación es decir hoy iniciamos el curso político con un acuerdo que tiene un enorme valor político y social

demostramos que es posible hacer las cosas de otra manera recuperando como decía la utilidad de la política para transformar realidades injustas y tiene valor social

así es este acuerdo no es un cheque en blanco

pensado en función de las urgencias de un partido sino en función de las urgencias de la sociedad vasca

muy vigilantes de su cumplimiento de que se cumpla punto por punto

y en todos sus ámbitos los socialistas vascos no somos tan presuntuosos como para decir que gobernamos desde la oposición

que gracias a este acuerdo ustedes van a gobernar con buena parte del programa de los socialistas pero sí puedo decir que somos un partido

de la política vasca porque hacemos propuestas de país y no propuestas partidarias para nosotros la prioridad es salir de la crisis y avanzar más en calidad de vida en bienestar en igualdad entre ciudadanos y ciudadanas

como no podía ser de otra manera pero garantizamos que todos somos iguales en derechos y en oportunidades

lo que conseguimos con este acuerdo que hemos firmado el pasado lunes y por eso vamos a seguir así vamos a seguir haciendo una oposición responsable y de país

reales de la ciudadanía no en función del revanchismo o el resentimiento vamos a hacer una oposición que no deslegitima a un gobierno vasco salido de las urnas

para que empiece a funcionar los socialistas vascos somos un partido

para hacer país mira a mí me gusta la frase con la que se cierra el primer libro editado en euskera

ojalá a este humilde comienzo le siga

latín el primer libro editado en euskera acaba en latín

de un ciclo político de desencuentros y de enfrentamientos entre vascos porque juntos tenemos que construir euskadi

el modelo de convivencia que define para cerrar el ciclo terrorista cuál es el modelo de autogobierno que defiende para que todos podamos compartir un futuro común sin exclusiones

pero superar no quiere decir enterrarlo en el olvido solo reconociendo nuestro pasado podemos construir otro futuro sobre bases más democráticas

que las grandes verdades son siempre simples y tenía razón

en euskadi ha habido personas que han matado al que pensaba diferente ha habido personas y grupos que han apoyado y que han fomentado el asesinato político en euskadi

lo que pasaba y ha habido resistentes ese es nuestro doloroso pasado un pasado que tenemos que asumir y superar juntos pero solo lo podemos hacer

desde la firme voluntad de construir una sociedad diferente y plural he repetido muchas veces que la democracia no es una ciudad amurallada y cerrada sino que está abierta a todos los que asumen sus valores sus principios sus reglas y quieren participar de un futuro compartido

estamos más que dispuestos a ayudar a todos los que busquen su entrada en esa ciudad democrática pero no vamos a abandonar nuestros principios y nuestros valores

al mundo de la violencia se sientan a gusto haciéndonos a todos los demás comulgar con ruedas de molino y es que a ese mundo hay que pedirles y les pedimos algo sencillo y simple

la responsabilidad de su pasado que rompan con los apoyos que dieron a la violencia en euskadi que se comprometan a trabajar junto a todos los demás

le llamamos compromiso con el suelo ético y conocen sus principios avanzar en la deslegitimación del terrorismo como un relato veraz sobre el inmenso daño que eta ha ocasionado en este país exigir y trabajar para que eta se disuelva y desaparezca definitivamente

y desarrollar iniciativas para sentar la convivencia sobre valores éticos y democráticos básicos desde políticas de memoria verdad y justicia lógico justo y razonable si lo que pretendemos es construir una sociedad decente y no una sociedad amoral eso no lo podemos hacer nosotros por ellos

tienen que hacer ustedes son los únicos que tienen la obligación de hacerlo

estaremos esperando con la mejor de las actitudes pero les tengo que decir por poner solo el último ejemplo que no son admisibles declaraciones como las realizadas esta misma semana

afirmando que los políticos debemos crear las condiciones para que eta no tenga razón de ser porque qué significa esto que hasta ahora sí tenía razón de ser significa

que eta nos asesinara por pensar diferente mire esto es justo lo que no podemos aceptar lo que tienen que asumir y decirlo de una vez por todas

algo tan sencillo pero tan radicalmente ético y democrático como esto nada más porque esas declaraciones

mucho camino por recorrer que las propuestas que hemos trasladado al plan de paz y convivencia son absolutamente necesarias

en el camino de la convivencia por eso yo le pido lehendakari firmeza

los principios que conocemos como suelo ético sin merma sin acomodos y sin ambigüedades de ningún tipo porque es desde ahí desde donde debemos empezar a caminar

cuál es la propuesta real que encierra eso que usted llama nuevo estatus político porque no es lo mismo una cosa que otra no es lo mismo sumar

no es lo mismo aunar que enfrentar mire señor lehendakari yo quiero ofrecerle

también en esto de acabar con los quince años de desencuentro la oportunidad de no volver a eso que se llamó el pacto de lizarra un pacto

que intentó construir euskadi únicamente sobre principios nacionalistas marginando y expulsando a todos los que no compartíamos la misma forma de entender la identidad ese pacto fracasó porque la sociedad vasca no quiere de ninguna manera enfrentamientos

los socialistas sin embargo nos ofrecemos para fomentar

de la voluntad de seguir viviendo juntos por muy distinto que pensemos señor lehendakari españa no es la enemiga de euskadi y los nacionalistas vascos no son mis enemigos al revés yo quiero hacer país con ustedes

entre todos quiero que sigamos conviviendo juntos

tenemos que pactar cómo seguir viviendo juntos respetando a cada uno su propia identidad porque euskadi va a seguir siendo diversa y plural cualquier intento homogeneizador a fracasado y fracasará porque

porque la identidad no es algo que se pueda votar en los parlamentos

y si entendemos esto si asumimos nuestra pluralidad y diversidad como una de nuestras mayores riquezas

sumarlas hacer participes a todas ellas

reforzar la convivencia de los distintos tratándolos como iguales señor lehendakari le ofrezco la oportunidad de iniciar un nuevo tiempo de unidad

un tiempo de superar enfrentamientos y lo digo desde el convencimiento sin cartas ocultas porque creo que la sociedad vasca nos exige un acuerdo entre diferentes un nuevo tiempo para trabajar juntos no para enfrentarnos

le digo que si usted y su gobierno intentan sacar de nuevo del cajón planes soberanistas unilaterales nos tendrán enfrente con la misma convicción y firmeza

entre la ciudadanía vasca hacer país entre todos nunca unos contra otros esa va a ser siempre nuestra posición y acabo

saldrá adelante que juntos saldremos de esta situación

reconociendo como un valor positivo y fundacional de la euskadi política la pluralidad y la diversidad identitaria

donde se garantice la igualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades se garantiza desde los servicios públicos universales porque donde la salud tiene un precio que muchos no pueden pagar no hay igualdad ante la vida porque donde la enseñanza tiene un precio que muchos no pueden pagar los humildes vivirán en permanente desigualdad la carrera de la vida

estamos viviendo momentos muy difíciles para muchas personas y familias

pero nosotros defendemos que los esfuerzos deben ser compartidos y bien repartidos

y no pueden hacer más y también hay otras que pueden hacer más en estos momentos en los que realmente es necesaria más que nunca

yo estoy convencido de que podemos estoy convencido que la inmensa mayoría de la ciudadanía está dispuesta a colaborar a arrimar el hombro si sabemos hacia donde queremos caminar

de que esta legislatura puede ser la entrada de euskadi en el nuevo siglo de forma definitiva estoy convencido de que nuestro pasado doloroso de violencia y de enfrentamiento puede finalizar con memoria justicia y democracia

y quiero decir a la ciudadanía vasca y a usted lehendakari que mi grupo no va a cejar en el intento estaremos todos los días dispuestos a ofrecer nuestra mano tendida y a coger también otras manos que tengan este mismo objetivo para euskadi y para su ciudadanía porque para eso somos los socialistas vascos eskerrik asko

españa tiene una deuda pública de novecientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta y ocho millónes de euros que supone

y si le añadimos la deuda privada llega hasta un billón de euros que viene a ser más o menos como el doscientos por ciento del pib el propio partido socialista obrero español dice que cada hora españa su deuda en dieciséis millónes de euros y según los parámetros de la unión europea el tope de la deuda admisible no debe superar nunca

y como digo españa tiene el noventa y dos coma dos por ciento de deuda es una deuda

la economía no puede disociarse de la soberanía semejante dependencia económica implica una pérdida de soberanía a manos de los acreedores que pueden imponer criterios establecer políticas

está en entredicho y no es un criterio es un hecho no es soberano un país que es obligado a cambiar su propia constitución para satisfacer intereses ajenos euskal herria no puede ceder soberanía a un país que ni siquiera es dueño de sí mismo

honelako esaldia españa no es sinónimo de seriedad no es sinónimo de rigor presupuestario no es sinónimo del control del déficit

sí podemos abordar ese desafío con garantías y nos tendremos que poner de acuerdo

sigue adelante la ponencia de esta casa hemos hecho todo el esfuerzo posible para continuar también en este foro y no siempre ha sido fácil

han decidido que la democracia es que los demás asuman lo que digo yo y si no no juegan si décimos lo mismo que ustedes ante este momento determinante las mismas actitudes que tienen ustedes nos convertimos en ustedes y tendrán que comprender nuestra reticencia cuando no se quiere hablar excusa es válida sin embargo cuando se quiere hablar cualquier obstáculo es inútil y en esas estamos

ni de cualquier otra donde vaya a tener como objetivo

este país ha sufrido una verdadera tragedia de violencias que han dejado multitud de víctimas que merecen todo el reconocimiento reparación y garantías

independientemente de quien ha sufrido el ataque y de quien lo ha producido que se sepa que la ética no puede sustentarse sobre una mirada

será completo o no será lamentablemente la violencia es algo actual no es algo del pasado en cárceles y tribunales políticos en comisarías y controles armados se mantiene todavía esa dinámica de violencia solo puede haber una condición solo una

y es la voluntad de estar ante actitudes de inmovilismo e incluso de involución de sabotaje

entre diferentes que es precisamente lo que esta sociedad nos pide eta ez dut amaitu nahi hizkuntzaz eta kulturaz hitz egin gabe